presidenta señor lehendakari la pregunta es si apoyará el gobierno vasco la celebración de la eurocopa dos mil veinte en bilbao es decir si apoyará el gobierno vasco que san mamés barria sea sede del campeonato europeo de selecciones

de momento es obvio que el partido nacionalista vasco no está apoyando a bilbao está haciendo de hecho todo lo posible para boicotear la designación

en bilbao o al menos parte del pnv parte del partido nacionalista vasco está tratando de boicotear esta designación en concreto el pnv más sectario el pnv más obtuso el pnv

boicotear la designación de san mamés podemos recordar las diferentes declaraciones que ha habido en las últimas semanas las declaraciones por ejemplo del diputado general de la diputación foral de bizkaia cuando dijo que si no es contra euskadi españa no debe jugar

y pidió perdón pero lo cierto es que al día siguiente realizó unas declaraciones que nosotros consideramos absolutamente inaceptables señor lehendakari

serio que el diputado general haya dicho lo siguiente con la selección española vendrían un montón de autobuses con banderas rojigualdas con aguiluchos y toros negros encima a tomar posesión de las provincias traidoras tendrá que haber un despliegue

con todas las tanquetas en la calle tendríamos un problema muy serio de orden público y de seguridad ciudadana

de la ciudad porque según él tendría que bajar las persianas para que no le rompieran los cristales usted señor lehendakari que dice ser una persona moderada seria y rigurosa le parecen serias estas declaraciones estos disparates

piensan que estas declaraciones ayudan a que san mamés pueda ser designada como sede conteste por favor a estas preguntas que yo creo que son muy concretas

una absoluta provocación son una absoluta irresponsabilidad declaraciones que crispan y que enfrentan a los ciudadanos y por lo tanto yo creo que usted está en la obligación de censurarlas de decir que no está de acuerdo con estos disparates usted que dice ser una persona modera y que

nos pide a los demás rigor y seriedad y que no digamos determinadas cosas qué le parece a usted estas declaraciones si quiere apoyar la designación de san mamés

censurar contundentemente estas declaraciones porque son absolutamente inaceptables eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna

señor maneiro digo ser y así me gustaría que me juzgarán porque así quiero ser

todas las instituciones públicas han apoyado y apoyan esta candidatura y a los hechos me remito señor maneiro a los hechos me remito

pero le invito que atienda a los hechos los hechos son concluyentes todo lo que hemos hecho en tiempo y forma como he dicho con anterioridad

apoyamos la celebración de la eurocopa dos mil veinte en bilbao en septiembre del año pasado dos mil trece dejamos constancia de ello y avanzamos

daremos un nuevo paso los hechos volverán a ser concluyentes y espero que también con éxito eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna

gracias presidenta mire usted como titulaba un medio de comunicación hace

en relación a esta cuestión el lehendakari remata la estrategia del partido nacionalista vasco para evitar que españa en san mamés yo creo que efectivamente si atendemos a todas las declaraciones habidas incluida alguna suya la conclusión es que ustedes no quieren que bilbao sea sede esta es nuestra conclusión usted mismo dijo que la candidatura será para acoger partidos de euskadi esta declaración

que es boicotear que san mamés pueda ser sede

yo le hago un pronóstico y es que bilbao será sede españa jugará como local señor lehendakari y el evento será un éxito económico

económico y deportivo y españa jugará como local en bilbao eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

tiene que ser en base a lo que digan los medios de comunicación y la interpretación de los medios de comunicación como hace usted pues tendré que llegar a la conclusión de que usted me tendrá que llamar mentiroso como en alguna ocasión me ha llamado desde esta misma tribuna sí en relación a los recibimientos supuestos

salidos como consecuencia de la sentencia del tribunal de derechos humanos por la doctrina parot cuestión que ha sido demostrada incluso en fechas por lo que ha sido

yo quiero que euskadi juegue y no sé si es oficialmente podrá participar por si se clasifica o no porque también le invito a usted a pensar en el formato de la eurocopa dos mil veinte que no es el mismo formato que los que hasta ahora han sido eurocopas o mundiales como para pensar si alguien es anfitrión o jugará como local en todo caso insisto

apoyar la eurocopa dos mil veinte es un objetivo importante pero no exclusivo tampoco para mí creo que es compatible con otro objetivo también importante por lo tanto también apoyamos que la selección vasca pueda participar en esta eurocopa dos mil veinte está claro señor maneiro que una cosa no quita la otra y le diría más

y viceversa la eurocopa dos mil veinte con la participación de la selección vasca supondría un éxito de mayor alcance para bilbao

este objetivo también lo compartimos creo el conjunto de las instituciones vascas creo que es un objetivo de país por el que merece la pena trabajar un objetivo

un objetivo que podría ser perfectamente asumible por usted y por su grupo como parlamentario vasco que es eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

banatzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta señorías consejeros buenos días
señora consejera el veintisiete de diciembre de dos mil trece convocó su departamento ustedes

como quinto punto del orden del día por cierto enviado veinticuatro horas antes figuraba plan de desarrollo rural dos mil catorce dos mil veinte

feader entre gobierno vasco y diputaciones con carácter decisorio no habiendo sido tratado en ninguna comisión anterior y sin ninguna previa el gobierno de españa para el reparto de estos fondos entre las comunidades autónomas ha utilizado indicadores económicos medioambientales y territoriales relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural competitividad de la agricultura gestión sostenible de los recursos naturales

aplicando la misma fórmula que la comisión utilizó para el reparto entre estados miembros señora consejera qué criterios ha tenido en cuenta el gobierno vasco para la distribución de los fondos feader entre gobierno vasco y diputaciones forales para el periodo dos mil catorce dos mil veinte

en qué justificamos por tanto el reparto que proponemos por una parte analizamos que la aportación del sector agrario y forestal al pib vasco

lo que corresponde como competencia a las diputaciones forales mientras que el de la industria agroalimentaria que corresponde al gobierno vasco es del uno coma dos por ciento si consideramos además que en las inversiones en desarrollo rural

políticas de innovación y demás así como de formación corresponden al gobierno vasco podríamos decir que aproximadamente el cincuenta por ciento debía ser o podría ser considerado que debía ser atendido por el gobierno además hemos considerado análisis del eustat

se observa que el peso de cada uno de ellos es en álava entre el cuarenta y tres cuarenta y cuatro por ciento

y gipuzkoa veintisiete veintiocho además hemos considerado el último periodo como se han repartido en el dos mil siete dos mil trece

independientemente de quién hubiera realizado las inversiones si gobierno vasco o diputaciones forales analizado en su conjunto

además los fondos de la ocm del vino se han visto incrementados en dos millónes por año y atendiendo a todos estos aspectos hemos realizado una propuesta que consideramos que era bastante adecuada sin embargo visto todo ello observábamos que álava aun así quedaba un poco desequilibrado y hemos tratado de corregir ese desfase

un uno coma cinco por ciento correspondiente a los fondos de gobierno vasco

de tal manera que álava gestionada por la diputación tiene un diecisiete por ciento

es decir las diputaciones gestionan el cincuenta y dos y el propio gobierno vasco un cuarenta y ocho y en general sumando las aportaciones de todos

sinceramente creemos que es un reparto justo y ajustado a la realidad territorial de cada uno de los territorios eskerrik asko eskerrik asko

señora consejera usted sabe que no ha habido criterios para el reparto porque así consta en el acta de la comisión que tuvieron el veintisiete de diciembre acta por cierto que no ha sido aprobada porque

así manifestaron que no estaba recogido lo que ellos expresaron por lo tanto señora consejera lo que es una realidad es que las diputaciones de gipuzkoa y álava

en este reparto porque históricamente están siendo perjudicadas y especialmente álava y manifestaron la necesidad de establecer unos criterios para el reparto

rentas además les pidieron un plazo para valorar la propuesta el gobierno se cerró en banda y no dio más opciones ordeno y mando el peso sectorial agrario más industria agroalimentaria en álava es del cuarenta y tres por ciento

antes ya el gobierno se adjudica así solo el cuarenta y ocho por ciento

tiene un peso sectorial agrario del treinta por ciento y se le adjudica el diecinueve coma cincuenta y seis

gipuzkoa y álava piden ampliar el porcentaje a las diputaciones además de establecer criterios objetivos porque de este reparto lo que sí vemos es que gobierno vasco y diputación de bizkaia suman

desde el grupo popular no podemos entender que el sector agrario en estos dos territorios y especialmente en álava esté siendo castigado permanentemente

hemos dado más fondos a la agricultura alavesa porque así lo hacen porque históricamente lo han hecho sin criterio a dedo hemos dado no hemos en base a unos criterios le corresponden un reparto no señora consejera

históricamente el gobierno es incapaz de ejecutar ese cincuenta por ciento históricamente los reparte a última hora de mala manera también sin criterios señora consejera

en este momento cómo va a repartir lo que no es capaz de ejecutar en este periodo

señora consejera históricamente no hay criterios y lo hacen a dedo

porque los criterios que aquí ha expuesto no los puso en la comisión

no me voy a repetir los criterios son los que le he afirmado pero sobre todo no se haga trampas al solitario por favor le he dicho que

es sumando diputación foral y gobierno vasco en ese sentido se ha realizado y eso es así

ha subido gipuzkoa en concreto por tanto no se haga trampas al solitario porque no es así

no lo digan ahora porque en diciembre la diputación aceptó la propuesta eskerrik asko eskerrik asko

en base a los objetivos mencionados hau da turistikoki

eta gaztelaniaz aipatuko dut kasu honetan la oficina de información turística

de forma permanente y dotando de alguna forma de un servicio de información tanto a los vecinos del municipio como a los que vienen de fuera beraz turistikoki

epsilon hiriko zambrana de miguel bravo orgüello

de una atractiva infraestructura destinada a diversificar la oferta turística onartzen da

gracias presidenta buenos días consejero hay personas que acuden a lanbide a pedir la renta de garantías de ingreso

y no les dicen mucho más o reciben contestaciones muy genéricas

motivación de la negativa clara hablamos de personas en muchos casos en situación desesperada

además de dejarles sin ingresos les deja indefensos el ararteko se ha hecho eco de este problema y lo que el ararteko

a los derechos sociales por efectos de la crisis y en una recomendación del mes pasado

que diga con claridad por qué se desestima cada demanda

porque con independencia de que hay que cumplir con la obligación marcada por el legislador de una forma clara estamos hablando de que con dicha resolución se está perdiendo un derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos

de cuál es la causa concreta de la denegación el defensor del pueblo vasco ha remitido una serie de recomendaciones al servicio vasco de empleo para que reconduzca

se trata de evitar las situaciones de indefensión que se generan dado que la ausencia de información concreta en su motivación en la redacción de los dictámenes

suspensión o denegación de la renta de garantías de ingresos no es objeto de esta iniciativa debatir sobre cuáles son las razones de la denegación el gobierno vasco estudia en cada caso los expedientes

razones de denegar o de aprobar los mismos en esta interpelación lo que estamos tratando es una cuestión de procedimiento formal

de las resoluciones negativas con el fin de evitar la indefensión de los ciudadanos a la hora de tener que recurrir la resolución denegatoria

según aprecian los técnicos del ararteko al examinar las resoluciones de lanbide

o denegaciones del derecho no suelen contener motivos concretos sino referencias muy genéricas así las personas afectadas desconocen

se les suspende o extingue el ararteko ha argumentado que la falta de información afecta al derecho que toda persona tiene a presentar alegaciones a una resolución denegatoria ya que si uno desconoce el porqué de la decisión de la administración difícilmente puede oponerse la misma en el defensor del pueblo se ha recibido quejas

en que se basan las resoluciones negativas es por ello por lo que el defensor del pueblo vasco reclama a lanbide que en la redacción de las resoluciones

que de las explicaciones de una forma fácilmente comprensible por los destinatarios consideramos necesaria una descripción concisa de los hechos redactada en un lenguaje fácilmente comprensible y además que recoja los preceptos legales en los que se fundamenta la medida adoptada

resoluciones negativas en supuestos de renta de garantía de ingresos solo de esta forma se puede garantizar un total respeto a los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad y existe una obligación legal de procedimiento administrativo de motivar

y en concreto dentro del artículo cincuenta y cuatro de la ley de régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento administrativo

que los escritos que se dirigen a las personas afectadas se haga una breve referencia de los hechos que causan esa decisión y de las normas aplicables al caso concreto o fundamento de derecho la finalidad perseguida por la motivación es en primer lugar evitar la indefensión y facilitar al ciudadano afectado la posibilidad de presentar

adecuados a las resoluciones que les perjudican utilizando la forma procedimental adecuada a cada caso y además esta motivación en segundo lugar para garantizar la imparcialidad de la administración y evitar la indefensión

esto además de evitar la indefensión del ciudadano evitará la anulabilidad del acto administrativo no suficientemente motivado en vía judicial posteriormente

le va a permitir sin más indagaciones recurrirla en vía administrativa por tanto es importante que a la mayor brevedad posible el gobierno adopte las medidas y dé las instrucciones necesarias a fin de que se motiven de una forma suficiente las resoluciones

tal como recoge la recomendación del ararteko de enero de este año que se incluya un relato de los hechos

y que se incluya también la justificación jurídica de las medidas adoptadas dentro de todas las resoluciones de una forma adecuada utilizando

para los ciudadanos y ciudadanas afectados por la denegación esperamos que el gobierno dé los pasos adecuados para subsanar esta situación y cumplir con la recomendación efectuada por el ararteko

y porque considero sinceramente que en su intervención

el servicio público de empleo lanbide antes de dar una respuesta a la interpelación sobre cuáles son nuestros propósitos para evitar la indefensión de las personas demandantes de la renta de garantía de ingresos

a la propia interpelación dice en su encabezamiento que la interpelación viene motivada por la falta de motivación de las resoluciones de lanbide en las denegaciones

se dice entrecomillado por denegar la renta mínima sin explicar los motivos estas dos afirmaciones no son exactas

las denegaciones sí vienen motivadas afortunadamente en el resto de la justificación se matiza esta afirmación y se señala que en opinión del ararteko no se explican de forma clara

es decir hay una motivación genérica que yo también comparto con usted que no es suficiente digo afortunadamente porque lo primero habría sido un incumplimiento más flagrante de nuestras obligaciones lo segundo

de manera suficiente puede estar sujeto a interpretaciones

que ya anticipo que comparto porque de la misma manera que nos emplaza a mejorar la gestión en esta materia también reconoce que el avance realizado en la gestión de lanbide

ha sido muy notable y así lo han reconocido desde la propia institución le recuerdo

se hablaba de descenso de las reclamaciones cumplimiento de los trámites de audiencia tramitación de la mayoría de los expedientes en el plazo legal establecido etcétera

hacía referencia usted en su justificación a las centenares de quejas que recibe el ararteko sobre esta materia según las fuentes que he citado

a cuarenta y uno al mes durante el pasado ejercicio dicho esto le diré que comparto las consideraciones realizadas por el ararteko en su recomendación

en nuestro complejo funcionamiento no tenemos a veces en cuenta que no todas las personas están familiarizadas con tales procedimientos o no tienen las mismas habilidades en ocasiones no nos hacemos entender adecuadamente y es nuestro propósito seguir mejorando también en esto porque es una obligación para nosotros

debe realizarse respetando plenamente las exigencias sobre la adecuada motivación de las decisiones que se adopten en materia de renta de garantía de ingresos y de prestación complementaria de vivienda estas exigencias son un mandato definido tanto por la ley treinta barra noventa y dos en su artículo

de renta de garantía de ingresos y normas complementarias de desarrollo en efecto la renta de garantía de ingresos constituye un derecho subjetivo de la ciudadanía que se encuentra en situación de carencia de recursos económicos cuyo ejercicio

por los defectos de los que pueda adolecer la tramitación que desde la administración se realice con esta finalidad

de tramitación de expedientes de renta de garantía de ingresos procesos que en cualquier caso solo pueden comprenderse si son contemplados en su totalidad en su complejidad y teniendo en cuenta el nivel de deterioro que presentaban a principios de dos mil trece podemos resumir estos avances en los siguientes hitos

en los procesos de suspensión y de extinción así como los de las de inicio de revisión de expedientes logrando una mejor y más fácil comprensión de los mismos así

persigue que las comunicaciones dirigidas a los interesados y a las interesadas resulten comprensibles al aligerarse

en segundo lugar reestructuración y mejora de la atención e información en las propias oficinas de empleo se ha logrado que actualmente en la práctica totalidad de los casos los tramitadores puedan informar de primera mano de las razones de suspensión con el máximo grado de detalle

las que realizan la tramitación de los expedientes de suspensión o extinción de las prestaciones en caso de que la tramitación se haga desde otras instancias administrativas

de rgi de lanbide fundamentalmente desde los servicios centrales

para que toda la información que explique las consideraciones tenidas en cuenta para el dictado de la resolución o inicio del procedimiento esté accesible para cualquier tramitador

se han realizado también diversas jornadas técnicas con enfoque práctico a los tramitadores abordando la motivación de las resoluciones y otros aspectos de procedimiento

se realiza un control de calidad de las motivaciones no obstante compartimos también la idea de que aún no hemos finalizado este proceso de mejora

tal y como se evidencia en la reducción de quejas por este motivo debemos seguir incidiendo en el perfeccionamiento de la gestión ya que todo ello es especialmente sensible

actualmente en aras a seguir con la mejora que perseguimos se está revisando el sistema informático que facilita la motivación de las resoluciones

por otro en el que por un lado la tabla de motivos sea cerrada a un diálogo previamente definido con un procedimiento de mantenimiento de la misma

y nueva redacción de las causas genéricas de denegación suspensión extinción o modificación de las prestaciones con referencia concreta

que se ha incumplido y artículo en que se recoge para como usted decía en su intervención no causar indefensión a aquellas personas que se acercan a nuestras oficinas que además posibilite la adición de otra información de detalle

ya que determinados motivos además la requieren de manera obligatoria esto permitirá conocer con mayor precisión las razones concretas de una determinada denegación de una suspensión de una extinción o también de la modificación de las prestaciones posibilitándose así una adecuada defensa de los intereses del titular de la prestación

asociada al nuevo catálogo de motivos la referencia a los preceptos en los que se va a sustentar lamotivación en consonancia como ya hemos anticipado con lo exigido por el artículo cincuenta y cuatrobatgarrena

de veintiséis de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común con estas medidas que estamos desarrollando que se están implementando y con las que ya hemos puesto en marcha nos gustaría comprometernos en esta cámara para que

los titulares y beneficiarios de rgi puedan conocer

las razones que justifican cada acto administrativo en cuestión asegurando de esa manera su derecho de defensa y como consecuencia su dignidad

gracias presidenta consejero quiero hacer hincapié que esta recomendación del ararteko es

y dentro de la misma hace referencia a denuncias aunque sin especificar exactamente qué denuncias pueden ser de unos periodos u otros yo creo que

yo creo que lo que hay que hacer es mejorar y hacernos entender la administración de una forma adecuada

puedan entender mejor las resoluciones que nosotros hacemos y eso es lo verdaderamente importante y es lo que recoge la recomendación trasladada

y de la necesidad de motivar las resoluciones de la administración debiendo incluir esos hechos y los fundamentos de derecho de las resoluciones administrativas

pero esa motivación por parte del ararteko no se consideraba suficiente y es bueno cambiarla es correcto por tanto motivarla mucho más especificar mucho más cuáles son esas razones y eso es lo verdaderamente importante el señor consejero nos ha transmitido que ya están poniendo

adecuadas para cambiar las motivaciones de las resoluciones yo creo que esa es la finalidad perseguida por esta interpelación

y que esa modificación se concrete y se produzca lo antes posible es importante que todas las

en este sentido para mejorar y las motivaciones de las resoluciones pueden necesitar cambiarse o bien por cambios de normativas

suponer o pueden ser complejas a la hora de ser entendidas por los ciudadanos y es bueno cambiarlas y facilitar su comprensión por los mismos

me doy satisfecha con que se adopten las medidas oportunas y adecuadas

para que esto se subsane en beneficio de todos los ciudadanos nada más y muchas gracias eskerrik asko

lo que manifiesta en su intervención la voluntad de mejora por parte de lanbide creo que es

del último año comparto también que este es un objetivo que deben pretender todas las administraciones públicas pero

debiera producirse un plus añadido porque nos dirigimos en muchas ocasiones a personas en un grado de vulnerabilidad

que requiere de una cercanía especial por parte de la administración y ese va a ser nuestro objetivo

no generar indefensión sino que procurar una explicación adecuada a veces difícil porque el lenguaje comprensible y recoger textos legales a veces no suele ser elementos excesivamente compatibles yo suelo decir muchas veces que me gusta llevar a casa algunas de las

y ver si al leerlas son comprensibles la verdad es que la mayoría de las veces no lo son y creo que ese es un defecto que debemos superar sobre todo en este caso de personas especialmente vulnerables pero como le decía creo que ese proceso de mejora es constatable y

constatan esa realidad la situación de la gestión de las ayudas sociales avanza poco a poco hacia una mejora después

vasco de empleo en sus primeros meses de vida desde septiembre el número de quejas ha ido descendiendo

nada tienen que ver las cifras de expedientes registrados por el ararteko en noviembre del dos mil doce con las de noviembre pasado para el ararteko

en el caso de los plazos ya que se estableció que en dos meses había que resolver los expedientes en dos mil doce no se logró la mejora en los últimos datos

resueltas en plazo más del setenta por ciento las abundantes quejas por suspensiones en su percepción han empezado también a ser resueltas la razón es que lanbide ha empezado a garantizar un derecho de los ciudadanos el derecho de audiencia la audiencia antes de que se materialicen en definitiva la suspensión

previsto en la ley no se estaba cumpliendo el ararteko destaca la buena relación con el equipo del consejero de empleo juan maría aburto y con los responsables de lanbide

para resolver con agilidad lo relativo a las ayudas pone en valor el avance en la unificación de criterios entre oficinas

pese a todo el defensor reconoce que persiste

diferencias en la interpretación jurídica de la ley de garantía de ingresos e inclusión social pues bien constatamos el avance

con lo que falta el camino recorrido seguramente es importante pero creo sinceramente que el camino de mejora que nos queda todavía es mayor eskerrik asko

sí gracias presidenta señor consejero a ver si conseguimos aclararnos qué es lo que ha ocurrido

encargado por el gobierno vasco a una empresa externa voy a ver si

por un lado el gobierno vasco no incluye la ley de vivienda en su calendario legislativo se toma en consideración la proposición de ley de vivienda del partido socialista el gobierno solicita la realización de un estudio a una empresa externa un estudio que cuesta finalmente veintiuno mil quinientos treinta y ocho euros upyd recibe

el día veintinueve de enero de este mismo año el plazo de enmiendas a la proposición de ley del partido socialista que había sido tomada en consideración había finalizado ya el día trece de enero entendemos por lo tanto que el gobierno entregó o debió entregar este estudio al partido nacionalista vasco

del partido nacionalista vasco antes que al resto de grupos ya que las enmiendas presentadas por el partido nacionalista vasco son idénticas a las que planteaba

entendemos que se ha pedido un estudio a una empresa externa que ese estudio el resto de grupos lo recibimos una vez que el plazo de enmiendas ha finalizado sin embargo descubrimos que el grupo de los nacionalistas vascos ya tenía ese estudio en su poder

qué es lo que ha ocurrido en relación a esta cuestión eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok maneiro jauna en mi comparecencia del mes de febrero del pasado año ante esta cámara para explicar cuáles eran los objetivos del departamento de empleo y políticas sociales en esta legislatura dije que teníamos la intención de presentar un proyecto de ley de vivienda y lo dije también que lo pensábamos hacer a partir

presentado en el parlamento el pasado año por el gobierno del partido socialista con este objetivo nos pusimos en contacto con la misma consultora

a lo que nosotros considerábamos como necesidades actuales y prioridades de nuestro gobierno con los trabajos

el partido socialista con absoluta legitimidad registra en el parlamento una proposición de ley de vivienda

que era casi textualmente el documento que había presentado en la legislatura anterior el gobierno del partido socialista es decir era un documento del gobierno

se decidió por un lado no incluir un proyecto de ley de vivienda en el calendario legislativo del gobierno porque ya se había incluido en el parlamento

y por otro lado no abortar el trabajo que veníamos haciendo con la consultora trabajo que se estaba realizando a partir de lo que eran nuestras indicaciones

queríamos el documento porque este gobierno creemos también señor maneiro que tiene legitimidad para tratar de introducir modificaciones

que se tramita en el parlamento y eso solo puede hacerse de una manera a través del partido que lo sustenta por esa razón se le pidió

al grupo del pnv que propusiera enmiendas además de las que el mismo grupo quiso elaborar eskerrik asko

para entregárselo a un grupo parlamentario y que se ha pedido un estudio una vez que la proposición de ley del grupo socialista había sido aprobada nosotros pedimos al gobierno toda la documentación entregada por la empresa que realizó el estudio

en concreto pedimos este estudio el día trece de diciembre este estudio nosotros lo recibimos el día veintinueve de enero fuera de plazo tarde mes y medio después y resulta que el partido nacionalista vasco ya lo tenía en su poder esto

opinión es un absoluto escándalo pedimos ese informe pedimos ese estudio el día trece de diciembre el plazo de enmiendas finalizaba el día

lo recibimos el día veintinueve de enero y resulta que el grupo nacionalista vasco ya tenía ese estudio

el grupo nacionalista vasco se ha aprovechado de dinero público para presentar sus enmiendas a esa proposición de ley de vivienda

enmienda del grupo nacionalistas vascos esto es un escándalo y esto es malversación de dinero público señor consejero eskerrik asko

y solicitaría que retire las palabras finales que ha pronunciado porque no

malversación de fondos públicos en la actuación del gobierno el gobierno ha actuado con la legitimidad que tiene para

para trasladarle al grupo nacionalista al grupo que le sustenta para trasladarle no el estudio señor maneiro no el estudio sino las enmiendas

queremos introducir en la ley con absoluta legitimidad me preocupa yo le he escuchado atentamente señor maneiro le he escuchado atentamente

me preocupa mucho que usted no vaya al origen que es que se presenta en esta cámara una proposición de ley que había costado no veintiuno mil euros sino setenta mil

y que se presenta en esta cámara por un grupo concreto como proposición de ley y el gobierno no tiene legitimidad para intentar trasladar a su grupo parlamentario cuales quiere que sean las enmiendas que introduzca importante proyecto de ley creo que hemos actuado con absoluta legitimidad y le pediría por favor que considere seriamente las
manifestaciones que ha realizado en esta tribuna nada más muchas gracias eskerrik asko

buenos días muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios

de una u otra manera estamos en contacto o conocemos

en este país podemos decir que estamos preocupados con el proyecto de capitalidad cultural

tendrá lugar como expresión máxima en el dos mil dieciséis pero que ya desde la declaración de la misma pues tiene una andadura o debiera de tenerla

de dos mil catorce y este dos mil catorce tal y como hemos podido ver

en determinados documentos o informes pero también en lo que

a la organización de san sebastián dos mil dieciséis pues

de ese acontecimiento señora consejera dos mil dieciséis será el culmen

de la capitalidad cultural pero esa capitalidad cultural se debía de estar desarrollando ya

sobre proyectos y sobre realidades y la verdad es que no se ve gran cosa

usted nos dará luz porque el gobierno vasco lógicamente también está

que quiera que el éxito sea una realidad dos mil catorce debiera de

actividades expresiones concretas de esa capitalidad cultural pero hoy por hoy

señora consejera todos son incógnitas lo que estamos

posibilidades o vamos a ver o llegará pero de momento

para preguntarnos sobre esas cuestiones no sé si usted compartirá esta preocupación pero sí que

en este acontecimiento y en los eventos culturales que se organicen y en el éxito de los mismos y en la calidad de los mismos

donostia san sebastián será como he comentado antes en dos mil dieciséis junto con wroclaw en polonia capital europea de la cultura

capital europea de la cultura es una importante manifestación de la unión europea que pretende destacar la riqueza la diversidad de las culturas europeas y las características que comparten

entre los ciudadanos de europa según decisión polonia y españa son los dos estados miembros designados para acoger la manifestación capitalidad

octubre el comité de seguimiento y asesoría para la capitalidad europea de la cultura realizó un informe tras la primera reunión en bruselas de quince de octubre de dos mil trece bien será

la antesala ya de la capitalidad efectiva no en la valoración del comité hay que destacar pues algunas cuestiones

el definitivo programa y las concretas realizaciones de una manifestación cultural que tiene que tener un marcado carácter europeo y que debe de alejarse absolutamente de reduccionismos

todos entendemos que deba de ser así sobre todo en el ámbito de la cultura y en relación con lo que es la capitalidad europea

del comité asesor indican también que la distribución del presupuesto eso lo dice el comité asesor la distribución del presupuesto de la organización de san sebastián dos mil dieciséis se han destinado demasiados recursos a comunicación salarios gastos generales y administración en detrimento

importante vamos a dejarlo así es grave pero bueno vamos a entender que es el momento de hacer este tipo de afirmaciones para probablemente corregirlas pero ahí está esa afirmación del comité asesor se han destinado demasiados recursos a comunicación salarios gastos generales y administración en detrimento del programa artístico para una capitalidad cultural europea

y esta afirmación requiere que la organización de la capitalidad europea de la cultura en donostia san sebastián realice un esfuerzo

reforzar el programa cultural en las claves en las que se ganó la confianza inicial de la unión europea es decir esa confianza inicial ese equipo redactor esos esfuerzos que se hicieron al principio

no satisfactoria a la vista de esta cuestión pero bueno vamos

usted nos diga y a lo que vayamos viendo de ese desarrollo estamos en un buen momento

primero conocimiento de cómo están las cosas y segundo

de muy poco el mes que viene cuando se deberá presentar

sobre los distintos elementos relevantes para la realización óptima del proyecto de capitalidad presupuestos equilibrados programa cultural de dimensión estratégica estrategia de divulgación y comunicación etcétera

estas cuestiones con la preocupación con la preocupación responsable y desde aquí desde la máxima institución del país

oportunidad en la preparación de los programas y manifestaciones culturales de la capitalidad europea de la cultura dos mil dieciséis en donostia san sebastián nosotros hemos solicitado

hemos hecho esta interpelación en relación con qué criterios

que trabaja el gobierno vasco para la organización exitosa de la capitalidad cultural en

informe del comité de seguimiento y asesoría de octubre de dos mil dieciséis bueno ahí están las valoraciones todos hemos podido conocer he hecho referencia a algunas de las mismas y lo que ha dicho el comité en relación con algunas cuestiones

de que no se deben hacer un consejo de administración que debiera tener demasiados miembros parece que ese era uno de los propósitos iniciales de algunos de los miembros del consejo de administración del ayuntamiento de san sebastián etcétera y sin embargo sí que dice el comité que recomienda por su parte la constitución de un órgano consultivo

compuesto de universidades artistas empresarios etcétera en relación con la organización de las actividades

desde el ámbito de responsabilidad del gobierno vasco y del departamento que usted dirige la cuestión de la capitalidad cultural san sebastián dos mil dieciséis muchas gracias eskerrik asko

el gobierno vasco trabaja conforme a las recomendaciones de la comisión de control y asesoramiento de las capitales europeas de la cultura

como venía diciendo la comisión a instado a los cuatro niveles de gobierno

a liberar al equipo de gestión de los asuntos institucionales para que puedan concentrarse plenamente en la organización del excelente programa artístico de hecho fue esta la base que permitió a donostia san sebastián ganar el concurso y ser posteriormente propuesta por el ministerio como candidata

europea de la cultura en dos mil dieciséis los miembros de la comisión recordaron además a las administraciones públicas que la iniciativa de capital europea de la cultura

un aspecto que considero crucial remarcar y que debemos tener muy presente si queremos entre todos garantizar el éxito de nuestro proyecto un éxito que depende en gran medida

política ni el patronato ni el comité ejecutivo

el papel de los órganos de gobierno es en palabras de la comisión conducir ayudar y supervisar al equipo de donostia dos mil dieciséis

y concluían otorgando un elevado nivel de responsabilidad a las instituciones pero dejando claro

no consiste en el control o gestión a nivel de proyecto o actividad señor barrio la actuación que este gobierno lleva a cabo con respecto a la capitalidad

europeas de la cultura el gobierno vasco en su condición de patrono de la fundación donostia dos mil dieciséis combina el respeto al trabajo del equipo técnico en su desarrollo del proyecto original con la correspondiente financiación y la supervisión de dicho desarrollo

consiste fundamentalmente en cuidar con especial atención que los desarrollos y programas propuestos respeten los aspectos esenciales del proyecto como son la convivencia la creatividad social y la diversidad cultural y lingüística como factor de enriquecimiento social

se ha trabajado duro para conformar un equipo técnico capaz de reconducir de manera satisfactoria la situación del proyecto

ha sido larga y laboriosa desde el gobierno animamos y apoyamos a este equipo en su trascendental labor para desarrollar y gestionar el mejor proyecto cultural

cumpla sus objetivos de calidad europeismo y de impulsa protagonismo de la ciudadanía en los diferentes ejes

no hemos perdido de vista los objetivos marcados en el proyecto inicial los tenemos muy presentes a pesar de los reproches y las dudas suscitadas

y estamos confiados en que pronto podremos mostrar los resultados ante la sociedad

tenemos un equipo capaz de dirigirlo y gestionarlo así como de proporcionarle el necesario impulso disponemos incluso a pesar de la coyuntura económica que nos está tocando vivir

tal y como se acordó en la última reunión del patronato celebrada el once de diciembre de dos mil trece dicho programa deberá ser presentado al patronato a finales de marzo

será entonces cuando las instituciones podamos emitir un juicio claro y concreto sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos anteriormente citados por tanto

dejemos que centren toda su atención y dediquen su esfuerzo a gestar un programa cultural que consiga despertar nuevamente la ilusión de la ciudadanía de donostia y por qué no de todo el país vasco dejemos que el equipo directivo realice su trabajo con libertad sin ingerencias políticas sin ingerencias institucionales

para que puedan presentar el mejor programa cultural un programa capaz de poner en valor y movilizar la energía vital la capacidad creativa la inactiva emprendedora y el espíritu crítico para llevar a cabo un proceso de transformación social y cultural

un programa acorde al proyecto que fue elegido por el comité de selección de la capital europea de la cultura dos mil dieciséis de la unión europea eskerrik asko

a esas recomendaciones del comité de seguimiento y asesoramiento efectivamente en esta primera reunión y en este primer informe

importantes con ese estilo con esa forma de redacción pulcra o un poco equilibrada o un poco aséptica pero con cosas que yo quiero que tienen una trasfondo de preocupación que nosotros

de ver he hecho alguna referencia con anterioridad pero ahí está el informe ha habido determinada desconfianza pese a que en ese sentido también algo falla

eso ha ido así de eso también hemos hablado aquí bueno ha habido alguna valoración en relación con lo político que forma parte también de ese informe pero en cualquier caso tenemos que ser

desde el parlamento vasco y desde la responsabilidad o del control de la cultura pues de ver lo que se está haciendo

dejemos trabajar al equipo técnico ha dicho sí pero

no pero sí que hay que ser exigente y sobre todo usted en la definición de ese proyecto

en ese acontecimiento que corre algunos riesgos pero usted también lo ha dicho y también lo he dicho antes de localismo de reduccionismo y eso no va con el proyecto inicial que se aprobó

ante ese comité hablo de que un primer boceto del programa artístico en este mes tendrá conocimiento de cómo está si está elaborado porque tiene que ser revisado en marzo y junio de dos mil catorce y a partir de julio

estamos en esas no sé cómo controlará cómo encontrará

el propio gobierno vasco hasta la fecha en qué grado de colaboración está trabajando en este momento pero bueno quiero decir esto es importante para que nosotros también a través suyo conozcamos cómo está la cuestión

determinados miembros a la recomendación de ese órgano consultivo nosotros estamos y usted ha dicho bien y estamos completamente de acuerdo

en las claves además como fue el proyecto inicial nosotros estamos muy preocupados señora consejera con la politización

que bildu quiere hacer de la capitalidad san sebastían dos mil dieciséis muy preocupados ya lo estamos viendo en algunas expresiones

y yo quiero decirle a usted que por favor eso no serán injerencias el evitar la politización de esa cuestión eso será su responsabilidad

como consejera pero la de esas instituciones la de la diputación foral de gipuzkoa y el ayuntamiento de san sebastían a interpretar lo que fue la concesión de esa capitalidad cultural el comité en su informe insistía en una cuestión en que el programa artística y el plan de comunicación de la capital europea de la cultura deben

y la ciudad de los ciudadanos sean abordados apropiadamente para evitar cambios en ese planteamiento inicial

presentado en la fase de la solicitud incluidos los proyectos estrella bajo responsabilidad del director de proyectos

esa es la cuestión el comité percibe que se han destinados demasiados

cultural y a lo artístico esa es la cuestión el informe dos mil catorce sobre aspectos

esas son las cuestiones importantes de las que tenemos que tratar yo le pido ahora nos está informando que lo haga cumplidamente porque los vascos no solamente los donostiarras o los guipuzcoanos sino el conjunto de los vascos nos jugamos mucho con ese evento importante dos mil dieciséis y sabemos que gestionada y controlado por bildu tiene
muy malas perspectivas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea

y ha actuado siempre en consecuencia sin embargo detectamos cierta tendencia a tratar de otorgar un protagonismo y liderazgo excesivo de las instituciones

permítame que le recuerde cómo la comisión recordó a los patronos de la fundación que la iniciativa de la capital europea de la cultura no es un acontecimiento político sino cultural

el papel que las instituciones deben desempeñar en este proyecto consiste en dotarlos de los medios adecuados y suficientes

consiste en acompañarlo y afirmarlo tendiendo para ello los puentes necesarios consiste en facilitar la comunicación del proyecto a todos los niveles

y consiste en fomentar la implicación de los diversos sectores políticos de los agentes económicos y de manera primordial

y cómo no la participación de las instituciones está reflejada tanto en el comité ejecutivo como el patronato y es ahí donde nosotros tenemos nuestro

como ya le he dicho en la primera intervención en estos momentos el equipo técnico está elaborando el programa cultural que lo presentará en el mes de marzo al patronato y nuevamente le vuelvo a repetir dejémosles dejemos hacer

tengamos confianza cuando nos presenten nosotros seguiremos intentando apoyarles y acompañarles como hemos estado diciendo y viendo que realmente se está cumpliendo todo lo que se nos ha requerido desde la comisión horixe da gure eginkizuna europako kultura hiriburutzaren norbere proiektu propio gisa

este gobierno continuará desarrollando la labor de apoyo socialización impulso y vigilancia que le corresponde sin perder de vista el objetivo por el cual presentamos la candidatura donostia san sebastián y el territorio que representa esta candidatura debe formar un espacio en el que poder desarrollar proyectos

con una visión europeista sostenible y de futuro contamos con un proyecto sólido para ello tenemos un equipo capaz de dirigirlo y gestionarlo así como de proporcionarle un necesario impulso dejemos pues ahora que cada uno siga ejerciendo su papel

para poder presentar un programa acorde al proyecto que fue elegido por el comité de selección de la capital europea de la cultura dos mil dieciséis tengamos confianza en el equipo y no se preocupe que informaremos

todas también está el ministerio tanto en el comité ejecutivo como el patronato eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua

presento esta interpelación porque ha pasado ya más de un año de legislatura y aún así parece que estamos al principio seguimos

sin actuaciones que aborden los graves problemas de los distintos sectores culturales es una interpelación esta que está impulsada por la preocupación que tienen distintos agentes culturales

el gobierno vasco el mundo de la cultura está atravesando momentos muy difíciles los creadores

enormemente sin que el gobierno esté presente para apoyarlo

porque si algo ha caracterizado su actuación durante estos catorce meses es la indefinición de una política cultural y si no hay política cultural no hay criterio para decidir hacia dónde se dirige el dinero por eso la atribución de fondos que usted ha ido haciendo para las actuaciones

es errática pero no tener política cultural no es una opción o una prerrogativa consejera tiene usted la obligación de definirla sobre todo

por eso mediante esta interpelación sobre los objetivos que ha perseguido usted hasta ahora respecto al fortalecimiento del conjunto de los sectores de la cultura

y su departamento deje de estar difuminado hace dos legislaturas teníamos el plan vasco de la cultura

y ahora qué tenemos con qué marco ordena usted la política cultural de este gobierno con ninguno

diez años ni plan vasco de la cultura está aplicando consejera

un departamento lo sabe pero quiero recordarlo tiene fundamentalmente dos instrumentos para gobernar dos el boletín

o lo que es lo mismo las normas y la distribución de fondos la cuantía y su destino bueno pues como iremos viendo no han definido ustedes nada nuevo en cuestión

se los ha reducido principalmente a los sectores más débiles de la cultura

un año en el que ha repetido en varias comparecencias en este parlamento la expresión

pero pasa el tiempo y puede que analice pero no hace

sin poner en marcha algo que lo sustituya por ejemplo eliminó el bono cultura algo que funcionaba magníficamente muy valorado

con el pretexto de que iba a poner en marcha otra cosa lo ha dicho usted pero no lo sustituyó por nada produciendo un perjuicio económico importante al sector

usted de lo que menos se ha preocupado es del empleo cultural

porque la industria cultural está formada por pymes el noventa y cinco por ciento de esas empresas

y el ochenta y uno por ciento solo tiene uno o dos

de soportar una crisis como esta yo creo consejera que ustedes no son conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesa la cultura vasca es dramática con las instituciones se relacionan con los poderosos del mundo de la cultura

que está viviendo el mundo de la cultura el sector audiovisual por ejemplo está perdiendo puestos de trabajo y manteniendo otros muchos en situaciones muy precarias

sin crear una nueva medida de ayuda financiera a las productoras y sin tener en cuenta que hay producciones que no pueden adelantar fondos y que los bancos no conceden crédito a eliminado también las ayudas a las tv movies muy importantes para mantener empleo en el sector

un millón de euros menos respecto a dos mil trece las ayudas a la producción audiovisual y en cuanto a las salas de cine han desaparecido en dos mil trece y en dos mil catorce

para la digitalización y modernización del sector que además es obligada para ellos

entre dos mil trece y dos mil catorce desaparecerán dos coma dos millónes de incentivos a la producción individual esta

no tiene nada que ver con lo que dijo usted hace un año en su primera comparecencia en este parlamento señaló

culturales entre las que destacó la audiovisual en fin que a la vista de lo dicho me parece que en ese sector

también se refiere usted a que es realmente importante apoyar y expandir una red

y el año pasado ha dejado morir la secretaría que se encargaba de asesorar y dar asistencia técnica a esos centros también ha suprimido la partida destinada

así que el único impulso que recibirán es gracias a una enmienda de mi grupo a los presupuestos consejera no aprovecha usted siquiera el impulso de este parlamento que en mayo pasado instó por iniciativa socialista

algo tendrá que decir el pnv ante lo que voy a contar se comprometió a apoyar financieramente

no lo aprovecha y de paso no hace ni caso a este parlamento porque no ha hecho nada al respecto en el mismo sentido consejera cuál ha sido su aportación desde la cultura

ninguna el mantenimiento del empleo cultural en épocas de crisis no es su objetivo

no aparece empleo el mundo de la cultura o es empleo también industrial

más simbólico para dividir otra vez a la cultura suprimiendo o reduciendo las ayudas a las asociaciones que no son de su gusto algo hemos corregido

es kultur klub una iniciativa mixta impulsada por el anterior gobierno socialista y cuya parte privada es el propio sector ahí están

federación de libreros es evidente a qué se dedican y algunos más y usted está empeñada en cargárselo empeñada

igual que ha hecho con el bono cultura las dos herramientas más potentes que teníamos para incentivar el consumo cultural y facilitar la distribución de los productos culturales

a veces se ha referido usted a la crisis pero la crisis no puede justificarlo todo cuando entró el anterior gobierno el socialista la situación presupuestaria era muy difícil

catorce meses en resumen fueron en los seis primeros meses se invirtieron dos millónes de euros en el programa kultura bultzatuz

que promovió más de doscientos cuarenta actuaciones en la programación teatral merkagunetan que organizado con las asociaciones de comerciantes de euskadi

restantes se invirtieron otros seis millónes más en nuevos programas kultur klik eremuak primeras inversiones en fábricas de creación y la redacción de la orden de ayudas a tv movies que usted ha eliminado kultura bi puntu zero cine euskadi el

hay más lista en definitiva consejera se puede y se debe actuar para fortalecer a los sectores culturales aún cuando no haya mucho dinero

ni al empleo en la cultura qué hacen ustedes nada simplemente dejan que las cosas discurran administrativamente sin ningún salto de cualidad y apostando por el perfil más bajo que se conoce en el departamento de cultura

lo hecho que integre y que sea capaz de afrontar la situación de emergencia del sector de producción cultural con medidas que entre otros asuntos

presidente andrea no solo usted también yo todos y todas las presentes somos conscientes de la dificultad en que se encuentran los agentes y los diversos sectores de la cultura al igual que los demás ámbitos de la sociedad estamos viviendo momentos muy críticos sin embargo la cultura es vital para nuestra sociedad

así lo entendemos nosotros sabemos que la cultura es imprescindible para un desarrollo plenamente humano y una mayor cohesión social así mismo su incidencia económica cada vez más importante y cada vez más evidente hemos aprendido a valorar la repercusión de la cultura en la generación de riqueza

cuáles son nuestras actuaciones en el ámbito de la cultura una política cultural que articulamos entorno a dos conceptos clave

conceptos que atraviesan las principales líneas de actuación de este departamento ordenar significa clarificar y objetivar las distintas líneas de apoyo que tiene el gobierno aunar recursos y profundizar en una mayor colaboración y coordinación

buscando una mayor eficiencia en esta línea hemos redimensionado el mapa de subvenciones nominativas de manera que estas se destinen a agentes o proyectos estructurantes

paralelamente trabajamos para que los agentes reorganicen la articulación interna de cada sector aunando fuerzas así en el ámbito de la música las diversas asociaciones podrán agruparse en una sola oficina de la música musika bulegoa que permita una mayor coordinación interna y una mejor interlocución

estamos elaborando dos leyes cuya actualización resulta urgente la ley de patrimonio cultural y la ley de archivos y bibliotecas de euskadi

en la definitiva unificación de la red de bibliotecas de lectura pública con la incorporación a la misma de recursos tan fundamentales como los servicios de bibliotecas de bilbao donostia o santurtzi

esta labor de ordenación resulta fundamental para dar respuesta también a las políticas culturales

a través de su plan estratégico europa creativa su llamada a coordinar políticas de cultura de desarrollo económico y de hacienda es una invitación que no podemos desoír

todo lo dicho nos lleva al segundo concepto compartir partekatzea

esanguratsuak dira quiero destacar en este orden de cosas el plan kultura auzolanean que estamos desarrollando para redefinir el foro

recogiendo las aportaciones que supusieron el plan vasco de la cultura y el contrato ciudadano por las culturas así pues ordenar y compartir estos son los dos principios rectores

en el ámbito de la cultura el primer eje estratégico es la consolidación de las instituciones culturales se ha estabilizado la situación del museo balenciaga y se ha abordado la renovación de su equipo técnico y su dirección hemos consolidado la aportación a festivales tan importantes

a cuyo consejo de administración se ha incorporado el departamento de desarrollo económico y competitividad haciendo visible así la importancia de su aportación cultural y su retorno económico hemos apostado con decisión por el proyecto innovador de la restauración de la catedral santa maría por el museo artium de vitoria por la quincena musical de donostia san sebastián

tiempo trabajando con intensidad de forma discreta porque la reserva y la discreción son claves

con la familia chillida con el objeto de reabrir chillida leku apostamos por tabakalera y por el proyecto donostia dos mil dieciséis muchos de estos aspectos

lo sabemos pero son las instituciones culturales las que deben tener el protagonismo

constante y firme fruto de esa labor hemos inaugurado recientemente el archivo histórico de euskadi que supone una oportunidad de profundizar en la ordenación de los recursos documentales de la misma manera nos proponemos reforzar la red de bibliotecas públicas e impulsar el papel de la filmoteca de euskadi

como archivo musical y elemento fundamental para la conservación y socialización de nuestro patrimonio sonoro

como ya he apuntado antes la sociedad digital ha sacudido muchos de los cimientos de la actividad cultural creadores

y en esa transformación las instituciones políticas debemos acompañar y ayudar

para lo que se requiere del acuerdo con los agentes culturales se está haciendo y sus resultados se verán a partir de este año ejemplo de ello es el complejo proyecto de prestamo

estamos trabajando para articular plataformas tecnológicas que relacionen en todo lo que en arte en audiovisual

se ha ido digitalizando estos años y por último no podemos olvidarnos de la importancia del concepto de accesibilidad a la cultura que constituye nuestro cuarto eje

adquiere una importancia cada vez mayor kulturklik bezalako ekimenak funtsezkoak dira informazioa bateratzeko eta

en dos mil trece hemos desarrollado un proyecto digital de vinculación de los escolares al patrimonio

y por supuesto la accesibilidad es también una cuestión de apoyo económico fomentar el consumo cultural es necesario

mantener hábitos de consumo cultural es importante debemos diagnosticar la situación de la demanda cultural y del nivel de acceso a la cultura y establecer una estrategia de largo recorrido y de carácter integral para la activación eficaz de la demanda cultural

ordenar significa no alborotar y no empezar de cero si no es necesario compartir
en el presente pero también con el pasado anterior eskerrik asko uriarte andrea reyes jauna zurea da hitza

consejera me parece que todo lo que usted ha dicho y lo que yo he dicho

usted maneja con profusión el futuro prácticamente no cita el presente y desconocen en su departamento el pretérito perfecto el he hecho el he acabado he puesto en marcha eso lo desconocen repase

su intervención ha utilizado constantemente el futuro en ningún momento

el presente salvo para decir que está haciendo cosas para el futuro pero es que no estamos hace catorce meses ya la legislatura camina hacía el ecuador analizando pensando y prometiendo frutos de aquello que hace pero no tiene un plan estructurado que sirva para algo que actúe concretamente en algo y por supuesto no tiene nada nuevo que ofrecer

de que la cultura tiene graves problemas el tejido

ya pero es que usted no puede quedarse ahí usted es la consejera de cultura y usted tiene que dar soluciones podrá equivocarse pero tiene que actuar

tiene problemas el sector de la cultura basta con hablar con ellos y se quejan amargamente claro pero usted no puede decir que lo conoce usted tiene que decir qué va a hacer y hoy aquí no ha dicho

que sirva para algo ha comentado actuaciones concretas dispersas pero cuál es su política cultural cuál cuál es el marco en el que se mueve

está haciendo de choque sobre todo para permitir que se sostenga un tejido débil como le he dicho que está sufriendo enormemente y que supone

mucha riqueza cultural que se pierde cuando se debilita o desaparece dónde está lo que usted hace para eso a parte

de medidas aisladas dónde está el plan para

cómo puede reducir las subvenciones y decir que es importante y que está mal y habla usted de que están

para analizar el borrador que hace catorce meses dejó acabado el gobierno anterior oiga pues si catorce meses son para analizar un borrador y todavía lo están analizando

ese presente trabajar en la ley de archivos y bibliotecas

dice que se ha estabilizado el museo balenciaga sí como un moribundo en la uvi porque el museo balenciaga que estaba iniciando una velocidad crucero importante una arrancada muy vigorosa la legislatura pasada resulta que es el tercer era el museo el tercero en financiación con fondos propios nutrido por visitantes y los recursos que obtiene por sí mismo a parte lo que dan las instituciones el tercero después del guggenheim y del bellas artes y resulta que con problemas

de otro tipo hasta judiciales pero había cogido ya una ordenación un equipo directivo potente eficaz y

lo abandonaron por cuestiones dinerarias exclusivamente

es recortar gasto y otra cosa es abandonar en la cuneta un proyecto y cuando se dieron cuenta de que eso estaba muriendo se les iba por la bañera todos corrieron a meter algo de dinero para que se sostenga pero ahora

algo que el proyecto museístico es difícil ya que salga adelante y que tendrá unas exposiciones

y ahí estará lo que pudo ser y no ha sido dice

por los fuertes no por lo débiles por lo que más necesitan porque en diciembre le han dado doscientos cuarenta mil euros para funcionamiento

que tiene dificultades como los demás museos ha disminuido

pero tiene más recursos más capacidad de reacción que todo ese tejido disperso pequeño débil pero tan importante en nuestra sociedad que crea

y que es el verdadero tejido cultural de euskadi al que abandona es muy fácil hacer la foto
en las instituciones importantes que también tiene que ocuparse de ellas por supuesto eskerrik asko

perdón pensaba que estaba en pleno uriarte andrea

señor reyes aunque no sé si hablamos idiomas diferentes

o tenemos lenguajes distintos nosotros estamos trabajando usted no lo cree estamos en contacto con el sector usted no lo cree

realmente cuál es la política cultural y bien organizada y ordenada del departamento es cierto que hay mucho del trabajo que se está haciendo de forma silenciosa pero usted en su planteamiento a mí ha habido un momento que yo no sabia si me estaba encontrando en la comisión

de cada una de las partidas o tenía que estar hablando de política cultural es cierto que la economía acondiciona la política cultural pero entramos en política cultural en un marco de que es lo que yo le he explicado y otra cosa es entrar partida a partida

ahí yo creo que podemos tener diferencias

y por mi parte desde luego totalmente abierta a trabajar a colaborar

usted ha hablado del bono cultura del consumo cultural coincidimos

estamos ante un momento clave que resulta necesario buscar soluciones creativas sostenibles y duraderas no exclusivamente financiar una cosa que igual no funciona bien tampoco se trata de deshacer lo que ha hecho en la legislatura anterior todo lo contrario es aprovechar

hay que repensar la situación no es la misma la situación económica ha cambiado

estamos bastante peor entonces hay que hacer realmente hay que pensar y para pensar hay que hacer las cosas con calma no se puede decir

en lo que se refiere al consumo cultural creo que el informe de políticas de fomento del consumo cultural elaborado por el observatorio de la cultura en noviembre del dos mil trece se recogen bien algunas de las debilidades

un poco en ese estudio también para establecer en base a las debilidades detectadas y las nuevas ideas que se puedan plantear

el año pasado estuvimos trabajando en ese sentido no salió bien lo que estábamos pensado pero

pronto poder traerle unas nuevas políticas de apoyo comunicativo y económico al consumo en ámbitos diferenciados

y vincularla mejor a los sectores y por supuesto que no sea exclusivamente en unas épocas del año que realmente muchas veces no necesitan tanto apoyo al consumo cultural como el resto de la anualidad usted ha hablado también de la financiación de las industrias culturales las industrias culturales están inmersas en una profunda transformación de sus modelos de negocio a lo que se suman las dificultades financieras

el gobierno vasco preocupado ha mantenido numerosos contactos para conocer diferentes modelos

con el marco general de la unión europea entre las recomendaciones más importantes está la necesidad de tejer medidas coordinas entre las áreas de cultura

por una parte se han reforzado las ayudas económicas ofrecidas al sector mediante las convocatorias

se establezcan a través de las ayudas de financiación existentes para lo cual se está trabajando de manera coordinada con el departamento de economía y hacienda así como con la sociedad de garantía recíproca elkargi con el fin de responder

en relación con las subvenciones nominativas por citar alguno de los múltiples temas que usted ha citado señor reyes usted sabe perfectamente que este parlamento como bien lo recuerda usted aprobó conjuntamente en junio de dos mil trece una moción presentada por upyd

los socialistas en relación con la política de subvenciones planteada por el departamento esta misma semana

el gobierno vasco sigue escrupulosamente los criterios acordados en el parlamento en consecuencia las subvenciones que se otorgan a los distintos agentes culturales se realizan mediante los procedimientos ordinarios

simplemente abrir la disposición a la colaboración a seguir trabajando conjuntamente

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

señora consejera bueno desde luego esta iniciativa no

profundizar en la polémica una polémica que en este momento se genera en san sebastián incluso en los propios partidos políticos o sea que

y en este caso fundamentada en una resolución

el ararteko hizo pública como resolución en relación con la incoación del expediente de calificación de bien cultural del cine bellas artes de san sebastián

departamento de educación política lingüística y cultura debe de proceder el correspondiente expediente de calificación de bien de interés cultural para el edificio

a la vista del informe de la dirección del patrimonio cultural que reconoce que el edificio

culturales suficientes para poder formar parte del patrimonio cultural vasco en los términos previstos en el artículo once de la ley

de patrimonio del país vasco efectivamente hemos podido ver hemos analizado también el informe

departamento y es claro es inequívoco en relación con la cuestión también dice que

de san sebastián el régimen de protección provisional a los efectos de la declaración de la situación legal

previsiones del en tramitación bueno ya hemos visto que por ahí el ayuntamiento ha ido dando pasos

una nueva realidad no y también decía el informe del ararteko en la resolución del ararteko que durante la tramitación

establezca un proceso de participación con las partes directamente interesadas

y con la concertación con las administraciones concernidas ayuntamiento de san sebastián diputación foral de gipuzkoa

establecer un régimen de protección y de uso que permita su puesta en valor y para ello incorporar un programa de financiación y de prioridades que eviten su destrucción hay una

y en ese sentido al apelar el ararteko a su propia capacidad de actuación nosotros le décimos

algunos pasos en relación con la redacción del con qué criterio valora el departamento que usted preside

de dos mil trece muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

gure abenduko idatzian el gobierno vasco mantiene su postura con respeto al valor cultural del edificio bellas artes de donostia sin duda alguna

para formar parte del inventario general del patrimonio cultural vasco en todo caso

debate motivado en gran medida por la preocupación existente con respecto al estado de conservación del edificio y las posibles consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad patrimonial

le recuerdo además que esta fue precisamente la petición del parlamento

testigos de que hay un debate interesante incluso los partidos políticos con

del edificio de bellas artes ligado a la cultura ligado al urbanismo y ligado al cine

derribo del edificio del cine de bellas artes y construcción de un hotel bueno ahí está la cuestión que hay que encauzar con

y con lo que el propio gobierno vasco dice que el edificio es sin duda portador

como constructivos tipológicos urbanísticos y significativos como para formar parte del patrimonio cultural vasco en categoría de documento ahí está una clave que ustedes van a tener que despejar muchas gracias

supondría que se conservaría la fachada los paños de sillería de la planta baja y el chaflán

sin embargo dicho debate ha sido aplazado a petición de los grupos de la oposición

el gobierno vasco considera que el nivel de protección propuesto por la junta de gobierno municipal resulta razonable y proporcionado al valor cultural del edificio

este ejecutivo procederá a la apertura del expediente para descripción del

sí gracias presidenta señora consejera e i te be se ha convertido en un instrumento al servicio del nacionalismo vasco

lo fue siempre ha actuado de esa manera pero lo cierto es que durante este primer año de legislatura digamos que ha tomado nuevos bríos y está a la vista de todos todos podemos verlo todos los días cuál es la forma de actuar y de comportarse de e i te be

al servicio del nacionalismo vasco ese es su máximo objetivo

denunciarlo y no vamos a parar de denunciarlo hay múltiples de ejemplos los que habitualmente escuchamos y vemos e i te be lo sabemos perfectamente

a determinados temas el tratamiento informativo dado por ejemplo a las excarcelaciones producidas como consecuencia de la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina parot la temática elegida en sus diferentes

en fin siempre prefieren hablar de presos de eta siempre prefieren hablar de política penitenciaria siempre prefieren hablar de los actos

conocemos la cobertura informativa de los actos que lleva a cabo el partido nacionalista vasco la labor de los profesionales del ente al servicio del nacionalismo vasco la elección de los tertulianos y los colaboradores

los debates planteados en las diferentes tertulias la forma de encauzarlos la forma de teledirigirlos en fin las entrevistas que realizan incluida a un terrorista excarcelado y no arrepentido que insultó a las víctimas en la sociedad democrática la negativa de e i te be a dar voz a las víctimas del terrorismo en fin lo conocemos perfectamente bien y usted también por mucho que venga aquí a disimular que es lo que posiblemente haga un caso por ejemplo

por el pnv y eh bildu afirma que ha sido todo muy duro pero estamos todos muy contentos en fin es un simple ejemplo pero los hay a decenas todos los días del año por lo tanto tenemos una e i te be todos los días para fabricar nuevos ciudadanos nacionalistas y para sustentar el proyecto político del nacionalismo y esto es una vergüenza inaceptable

si tiene la dirección de e i te be intención de tomar medidas para cumplir su compromiso de servicio público garantizando una información verdaderamente objetiva
y plural sabemos que no pero se lo preguntamos a usted eskerrik asko maneiro jauna

presidente anderea permíteme en primer lugar señor maneiro

para contextualizar la contundencia de su argumentación las numerosas intervenciones que usted manifiesta se limitan en realidad a tres

entrevista al expreso oskar abad cuestión que fue abordada en un pleno de control por esta consejera giza katea

que también ha sido debidamente explicado por mí misma en la comisión de control de e i te be precisamente este lunes por la tarde y por último

con motivo de la manifestación del once de enero en el programa

cuestión que también ha sido explicada y cerrada a nivel de consejo de administración y también en la comisión de control de e i te be el lunes por la tarde me parece excesivo por tanto

y utilice una lógica deductiva tan aplastante de estos tres capítulos puntuales debe recordarse que en el tiempo de esta nueva dirección

noticias de actualidad no al servicio del nacionalismos vasco

y cuando se dan errores toca sencillamente reconocerlos analizarlos y adoptar los protocolos preventivos necesarios para evitar su repetición edozein kasutan

berehala zuzenduko dira ardura handienean en ese sentido hoy mismo y aquí

garantizando así el desarrollo de la misión establecida para e i te be en la propia ley de creación eskerrik asko uriarte

no son momentos o capítulos puntuales no son tres momentos o tres capítulos puntuales es toda una estrategia diseñada para colocar y poner a e i te be al servicio del nacionalismo vasco que viene de muy atrás es una estrategia diseñada ese es el compromiso que tiene el partido nacionalista vasco utilizar e i te be a su servicio y para defender su causa no son tres momentos y tampoco son errores no estamos hablando de errores si e i te be sigue así e i te be sobra

no nos sirve porque hacen falta medios de comunicación objetivos y veraces que realicen y presten de verdad un servicio público y es justo lo que no tenemos en absoluto no lo tenemos en absoluto el problema es que la dirección es nacionalista y los profesionales son nacionalistas
y por lo tanto utilizan a e i te be a su servicio eskerrik asko maneiro jauna

eta baita etbren langileak ere considero y no puedo compartir con usted la estrategia que usted dice que hay detrás no la comparto en absoluto su lógica deductiva no tiene nada que ver con la mía por menos y yo creo que con la de muchos más

que algunas de las afirmaciones realizadas recientemente criticando la labor de los profesionales han estado fuera de lugar y quiero hoy defender nuevamente la profesionalidad de la plantilla de e i te be aún y cuando se puedan cometer errores lo importante es

y no es una estrategia eskerrik asko eskerrik asko uriarte

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

señores consejeros señor darpón bien nosotros tratamos de presentar esta

constructivo como entendemos fue el espíritu que guió la presentación del buen gobierno de las recomendaciones que en el gobierno anterior

con algo que era eminentemente bueno entendemos para el sistema

una vez transcurrido un año de legislatura y ver cómo el departamento de salud que usted preside pueden entender

que hilan con esa presentación del dos mil once efectivamente como se explicó allá por marzo del dos mil once en la comparecencia en la que se presentó este en este parlamento esas recomendaciones eso que se dio por llamar código de buen gobierno

entonces el consejo asesor del buen gobierno pues que se creo por del departamento de sanidad con profesionales con expertos en sanidad

vimos que efectivamente había cuestiones interesantes sobre las que

trasladar desde lo teórico a lo práctico que es lo importante muchas veces en esta gestión la gestión la sanidad como de otras cosas en este caso de la sanidad

en profundizar en aspectos tan importantes como la transparencia como la democracia efectivamente o como la participación en conceptos generales

importancia tienen mucha importancia también en otras cuestiones como lo relacionado con el status del directivo sanitario bien

comisión de sanidad y consumo el anterior consejero pero fundamentalmente quien les acompañaba el presidente del consejo asesor del buen gobierno para la sanidad publica vasca

se entendía así y se dijo y se asumió también por quienes entendíamos aquella comparecencia de

de profundización en principios y valores ligados a la asistencia en salud buen gobierno de la sanidad y de los sistemas de salud planteamientos estratégicos para ello buenas practicas de gestión los órganos de gobierno en las organizaciones de osakidetza la profesionalización de la gestión los comportamientos

en la sanidad publica vasca la participación ciudadana el buen gobierno de las políticas publicas de salud eran elementos y son elementos aun esenciales

la actividad pública en este caso la ligada a la asistencia sanitaria y desde luego en aquella comparecencia y aquellas recomendaciones pues formaban parte de esos elementos esenciales

y desde luego que eran recomendaciones también fruto de un análisis exhaustivo y la comparación con lo que es interesante pues con otros modelos avanzados de gestión sanitaria

y algunas cuestiones teóricas que también pues siempre vienen bien este informe

institucional y organizativos que promuevan el buen gobierno y el otro era la

lo básico la buena gestión fundamentada en la ejemplaridad

la dignidad de las personas así como la calidad y la eficiencia de los servicios públicos porque siempre presiden cualquier actuación en este caso también

en otra legislatura está claro nosotros entendíamos que puede haber una reflexión por parte

del gobierno actual y de su señoría en relación con que no se puede desperdiciar

sobre el buen gobierno en el sistema de salud que se hizo con anterioridad

línea en la materia del análisis de las mejores practicas del buen gobierno existentes en otros sistemas integrados y en ese sentido como

y cómo se recoge el planteamiento que la comisión de sanidad en aquel caso ahora de salud y en aquel caso se sanidad y consumo recibió con fundamentalmente o mayoritariamente con agrado y satisfacción

en relación con la aplicación en el sistema público vascode las recomendaciones y orientaciones recogidas en el informe de buen gobierno

señor barrio egun on guztioi berriro efectivamente conozco que en marzo del dos mil once se presentó ante la que en ese momento era la comisión de sanidad y consumo de este parlamento un código de buen gobierno para la sanidad por parte del entonces presidente del consejo asesor del buen gobierno para la sanidad vasca

cabasés creo que es el que hizo el informe pero el presidente de la comisión creo que era el señor josé manuel freire para poner a sus señorías en antecedentes ya que han pasado casi tres años desde este hecho

había sido creado en enero del año dos mil diez por orden del consejero de sanidad y consumo

un secretario y ocho vocales todos ellos designados directamente por el propio consejero el informe

recomendaciones del consejo asesor sobre el código del buen gobierno en la sanidad pública vasca un documento que según su principal autor el profesor juan cabasés estaba abierto sugerencias y aportaciones y tal y como me han trasmitido en el momento de la presentación todavía el documento estaba

de construcción el borrador estaba pendiente del análisis de las autoridades del departamento de sanidad de la propia comisión así como de los colegios profesionales de asociaciones de consumidores del consejo económico y social de personal directivo de osakidetza y de otras instituciones cuya opinión se consideraba interesante

nuestros propósitos respecto a las recomendaciones recogidas en ese primer documento presentado entonces en la comisión de sanidad y consumo son es evidente que compartimos tal y como usted ha transmitido que se trata de un documento repleto de recomendaciones y de reflexiones acertadas

no llegó a cerrarse en su totalidad el documento preliminar que conocemos y que fue el presentado en el dos mil once tuvo en cuenta

en materia de buen gobierno se plasmaron casi literalmente y esa es una institución que para nosotros tiene credibilidad y consideramos sus informes

y de obligada referencia la semana pasada se presentó en europa el informe que el comité europeo para los derechos sociales ha elaborado analizando la situación del estado español en relación al grado de cobertura de los derechos sociales y sanitarios durante el año dos mil trece la política referente a la cobertura sanitaria de la comunidad autónoma de euskadi durante este periodo se señala como adecuada y junto a la de navarra referente al resto de las comunidades tal y como ha transmitido el informe de recomendaciones del consejo asesor sobre el código de buen gobierno en la sanidad pública vasca

una serie de medidas sobre buenas prácticas de gestión órganos colegiados de gobierno profesionalización de la gestión impulso de comportamientos íntegros asesoramiento y participación de los profesionales participación ciudadana todo ello completado con unos planteamientos estratégicos y una recomendaciones finales

en su presentación y no era otro que la gestión sanitaria basada en valores

que en euskadi la gestión sanitaria está basada en valores pero no desde ayer ni desde la legislatura anterior sino yo creo que desde hace mucho tiempo no es una afirmación gratuita

la honradez el bien común y la buena práctica que ha sido reconocido por instituciones públicas y privadas tanto del estado español como de otros países

en particular así también lo reconoció en su momento el propio consejo asesor

pero no pretendo regocijarme y transmitir que estamos parados ni que no se pueda ni se deba de avanzar

que sin duda tenemos no le quepa la menor duda de que utilizaremos todo lo que se aporte o se haya aportado en positivo para conseguir el objetivo de mejora

del consejo de europa o de las estrategias que se presentaron en el proyecto osasuna zainduz

de este parlamento y que después de casi veinte años todavía están vigentes le pondré algún ejemplo

reflejaba directamente dotar a la población de un sistema de protección de la salud universal solidario equitativo y de calidad

una organización más comunicativa flexible y responsable garantizar a los usuarios mejor trato médico y humano

de gran calidad estos objetivos que contaron y cuentan con amplio consenso los compartimos y los hacemos nuestros para avanzar en el camino de la mejor

en esta legislatura como usted conoce tan bien se ha aprobado un nuevo

para el conjunto del gobierno que es fundamentalmente sobre el que nos vamos a basar a la hora de aplicar la mejor gobernanza que seamos capaces de dar eskerrik asko eskerrik asko

señor consejero por la valoración positiva y constructiva que se realizó de ese esfuerzo que nosotros compartimos y desde luego apoyamos e impulsamos

es bueno seguir hablando de ello por eso también nosotros queremos estimular ese debate en relación con

que marca la gestión de lo público y más en este tema tan vinculado al ciudadano tiene razón no llegó a cerrarse del todo efectivamente en relación con ese documento existía como hemos podido comprobar un plan de divulgación de puesta con colegios profesionales

interrumpió la legislatura y supongo que algunas cuestiones afectarían

ahí está el documento ahí está el trabajo que nosotros pensamos y por eso

que también usted es sensible a eso pues no se debe desperdiciar y en ese sentido efectivamente

está ahí ha hecho referencia la verdad es que exactamente al plan osasuna zainduz fue el primer impulso me acuerdo que lo debatimos también como

grandes documentos sobre sanidad y sobre líneas estratégicas del sistema

en ese plan osasuna zainduz fueron presentadas y realizadas por este portavoz que les habla ya en aquel entonces efectivamente

el código ético vamos el código de buen gobierno las recomendaciones del buen gobierno están garantizadas por un equipo que hizo un buen trabajo

que coordinó o que presidió aquel equipo el que vino aquí a presentarlo fue

personas vinculadas a la gerencia de los hospitales presidentes del colegio

delegados de salud es decir verdaderamente el consejo de médicos de euskadi independientemente de que luego podía haber sido presentado y la verdad es que hubo una buena recepción a lo que fue

hubo una buena recepción fuimos testigos de ellos porque nosotros también hablamos con personas con profesionales de la salud

hasta los compromisos hasta las buenas prácticas de gestión hacia los órganos colegiados la profesionalización

y si esos eran interiorizados como lo son en la mayoría de los casos pero

en relación con esta cuestión y porque esté aquí y porque tenga protagonismo las recomendaciones del buen gobierno pues a raíz de esta interpelación

para profesionales para gestores para usuarios de la sanidad pública y desde luego también para el gobierno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna darpón jauna zurea da hitza

hicimos del documento es positiva nosotros también es uno de los documentos que pasamos al departamento de justicia y función pública para tenerlo en cuenta en la elaboración del nuevo código de ética

lógicamente esta legislatura vamos a partir del código de ética y buena conducta del que se ha dotado todo el gobierno y con el que todos los cargos

es un código inspirado en corrientes nórdicas y anglosajonas que busca mejorar la calidad del servicio público

a la ciudadanía tiene un valor que trasciende al sistema sanitario pues abarca la totalidad de la acción de este gobierno y también la responsabilidad de su acción

son la integridad la excelencia el alineamiento entre la política y la gestión el liderazgo y la innovación y los principios que promulga y con los que se compromete

la objetividad transparencia la honestidad la ejemplaridad

creo que el hecho de haber puesto en marcha este nuevo código la comisión de ética pública que se ha puesto en marcha también y que mana del mismo y el compromiso de todos los miembros y altos cargos con él hablan por sí solos de los propósitos del conjunto de gobierno y también del departamento de salud como parte del mismo con las recomendaciones y orientaciones que recogía el informe del buen gobierno coincido con usted y estamos convencidos de que el buen gobierno es muy importante y no es un tema sectorial del ámbito de la salud sino es una exigencia social para el conjunto de personas que tenemos responsabilidades públicas

de la confianza que nos ha sido otorgada besterik ez eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

sí gracias presidenta de nuevo traemos a esta cámara el asunto de las aportaciones financieras

y comercializadas por distintas entidades financieras evidentemente otra vez traemos este asunto a debate porque es un asunto que no se ha resuelto y a día de hoy sigue habiendo ciudadanos víctimas afectados por esta estafa y por lo tanto yo creo que la obligación de los parlamentarios la obligación de los partidos políticos es atender a este problema que nos parece gravísimo y

volver a preguntar al gobierno qué es lo que piensa hacer para resolver este problema qué es lo que el gobierno vasco va a proponer para ayudar a resolver los problemas que tienen

víctimas de un fraude y de una estafa masiva evidentemente se cumple prácticamente ahora un año

upyd registra en esta cámara una iniciativa en relación con este asunto seguiremos insistiendo seguiremos insistiendo porque además hay muchos ciudadanos que así nos lo piden esta misma semana nos hemos reunido con algunos de ellos y creo que merecen toda nuestra

ayudarles a resolver esta situación y no solamente resolver esta situación sino impedir que vuelvan a producirse situaciones semejantes y señalar también

a los responsables de esta estafa y de este fraude

no son participación social sino títulos de deuda perpetua y subordinada su duración es perpetua

se sitúan detrás de los acreedores comunes o por créditos ordinarios estamos hablando

personas que adquirieron la deuda perpetua treinta mil de eroski de fagor estamos hablando de miles de personas que han sido estafadas y se trata esto es lo que nosotros queremos defender la justicia

a la impunidad y del mismo modo que en su momento presentamos una querella contra bankia

nuestra aportación en este asunto es volver a traer este debate porque como decía no se ha hecho lo suficiente y los propios afectados los propios estafados siguen diciéndonos que el gobierno vasco no ha hecho ni de lejos todo lo que debería de haber hecho en todos estos meses en los últimos meses

hemos debatido sobre esta cuestión ya digo se cumple un año y los estafados siguen sin recibir soluciones justas y sin ser atendidos como merecen

del gobierno vasco hoy siguen siendo miles los ciudadanos estafados avocados a graves problemas económicos y a sufrir situaciones personales y familiares absolutamente desoladoras el problema fundamental es que toda la información de la que ahora disponemos

en todo caso un producto tóxico pues no tuvieron la información completa la información fue sesgada padecieron ausencia de información o información parcialmente contada o manipulada se trata por lo tanto de un producto legal aunque tóxico en nuestra opinión comercializado de manera fraudulenta

del fraude la comercialización y el contexto también en el que se puede producir esa comercialización y el propio producto cuyas características

el engaño no se les informó adecuadamente de que se encontraban ante un producto de alto riesgo con escasa o nula liquidez y perpetuo durante todo este tiempo

la estafa el engaño masivo y el fraude es decir nos hemos ceñido a contar los hechos y a exigir al gobierno al gobierno vasco aunque no solo al gobierno vasco que haga todo lo que esté en su mano para atender a estos ciudadanos estafados en los últimos tiempos ha habido ciertas

ahí sin ahorros o con los ahorros reducidos desatendidos y sin soluciones lo último que hemos podido saber hoy mismo es que una asociación se decanta por reclamaciones individuales ante juzgados de primera instancia para tratar de recuperar su dinero el día seis de junio de dos mil trece

a adoptar para paliar la situación de miles de ciudadanos vascos

se aprobó una enmienda transaccional cuyo punto cuatro decía textualmente lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco al establecimiento de un servicio de atención a los afectados por las participaciones preferentes o subordinadas o productos financieros bursátiles similares de entidades financieras y empresas donde se facilite

y medios necesarios para poder ejercer cuantas actuaciones judiciales sean precisas en demanda de sus derechos y si fuera necesario se articule también

judiciales le interpelamos señor consejero para que explique el cumplimiento del acuerdo del día seis de junio aprobado en este parlamento si es que efectivamente

estar de acuerdo con nosotros en que este acuerdo el gobierno vasco no lo ha cumplido eskerrik asko maneiro jauna